egun on guztioi lehendakari señorías hoy podríamos dar comienzo a este pleno como si nada estuviese ocurriendo a nuestro alrededor como si no estuviesemos sumidos en una anomalía democrática

dirigentes políticos representantes políticos activistas sociales han sido condenados a penas de prisión por llevar la democracia a su máxima expresión que no es otra

sapigueu que teniu la nostra solidaritat la nostra escalfor

honengatik ere por esto también es imprescindible como decía dar un salto en las políticas públicas destinadas a dar respuesta y resolver los problemas de los

y así queda más recogido en el acuerdo que hemos alcanzado hoy y que a nuestro entender supone un punto de inflexión en la acción de este gobierno porque como decía el gobierno vasco hasta la fecha se ha preocupado y dedicado más a hacer que hace o aparecer que hace que realmente

no son tontas ni mucho menos y de hecho es muy significativa esta tabla de retratos de la juventud que es la última publicación del observatorio vasco de la juventud de junio del presente año

curiosamente y décimos curiosamente porque quizá sea que en el apartado en el cual se valora la actuación del gobierno vasco en los últimos años en los siguientes temas

vemos que valoran de manera positiva lo que ha hecho el ejecutivo en temas como turismo cultura medio ambiente obras públicas e infraestructuras pero que

empleo y tenemos vivienda con un porcentaje de un veinte por ciento y estos son datos de una encuesta realizada a las personas jóvenes de este país

dicho de otra manera un ochenta por ciento considera que el ejecutivo vasco lo está haciendo mal enplegua eta etxebizitzan

zoriontasuna helburu qué datos de emancipación esperamos con una tasa de desempleo juvenil que aunque se ha visto reducida sigue siendo el doble de la media europea la tasa de desempleo juvenil sigue siendo el doble de la media europea cómo va a emanciparse la juventud con un salario medio que apenas alcanza los mil euros

y parcialidad en los contratos que parece que viene de serie cómo va a emanciparse la juventud con precios de la vivienda de alquiler prohibitivos como estamos viendo últimamente a pesar del lema a pesar de la estadística de mercados

se ajusta demasiado bien a la realidad de los precios del alquiler fuentes del observatorio vasco de la juventud basados en datos del eustat esta línea de aquí

es el porcentaje de sueldo que una persona asalariada de dieciocho a treinta y cuatro años debería destinar a pagar en solitario

en dos mil diecisiete los últimos datos que se recogen debería destinar el setenta por ciento de su salario para poder permitirse una vivienda en alquiler

y esto está ocurriendo mientras la evolución del porcentaje de personas jóvenes emancipadas en régimen de alquiler sigue incrementando y sigue con su tendencia al alza siendo en dos mil seis del diecinueve por ciento

casi se ha triplicado las personas jóvenes en esta última década

que optan por una vivienda en alquiler es lehen aukera una solución no un programa que en su escala básica establece como requisito para las empresas que esos contratos

al pago del smi español de novecientos euros

incentivando contratos de precariedad mediante ayudas y programas desde las instituciones públicas no podemos abramos los ojos de una vez y establezcamos medidas para que por lo menos nuestras personas jóvenes que tengan acceso a ese primer empleo empiecen cobrando mínimamente

al problema de la falta de emancipación en vivienda de alquiler

no creemos que sea se ha constatado de hecho gaztelagun ahora mismo se ha convertido en un problema para este ejecutivo

para incentivar el alquiler de vivienda libre entre las personas jóvenes ha sido un fracaso sin precedentes veintidos

algo más de trescientos mil se han ejecutado y una previsión de ejecución de apenas medio millón de euros de aquí a finalizar el año con las demandas aprobadas

de presupuesto medio millón más o menos se va a ejecutar algo más seguramente para final de año

pero sí evidentemente reformularlos tal y como recogemos en la enmienda transaccional y que estos sean además programas complementarios de un plan integral de emancipación

y además de no podérnoslo permitir nuestros y nuestras jóvenes no se lo merecen eta horregatik diogu gaurkoan

esa preocupación entendemos que la edad de emancipación en euskadi comparada con otros países

pues es infinitamente mayor con lo cual queda claro que todos tendremos que hacer una reflexión y más allá de eso ponernos manos a la obra para intentar que esto no sea así y dar una oportunidad

de este país lo ha dicho el señor estarrona existen dos pilares básicos o dos causas fundamentales que dificultan esa emancipación por un lado es la escasez de empleo

las estadísticas están allí los datos son objetivos y por tanto

para acceder a una vivienda entre otras causas bien por esa carencia de empleo estable y de calidad

que no les permiten acceder a unas viviendas que por desgracia tanto

en algunas provincias está claro que tenemos que apostar por nuestra juventud la juventud es el futuro de este país sin jóvenes en este país pues bueno tenemos un futuro un tanto incierto habida cuenta entre otras cosas que la pirámide poblacional que tenemos en euskadi pues no es precisamente la que mejor futuro nos augura por tanto como decía necesitamos de un compromiso pero no únicamente de un compromiso de este gobierno

mucho más amplio que aborde o que abarque a todos los ámbitos sociales de este país cómo son los empleos de nuestros jóvenes lo he dicho son empleos que en los que la edad media finalizar la formación pues es muy muy elevada

el porcentaje de empleo estable y de calidad entre esos jóvenes que tienen una formación entiendo yo que es aceptable que es óptima para acceder a un puesto de trabajo

muy pequeña y por desgracia la mayoría de ellos pues están sujetos a unas condiciones

que principalmente les dan poca estabilidad y eso provoca que los jóvenes vascos tengan pocos incentivos para

de una casa de un lugar en el que poder emanciparse cómo son las viviendas pues lo he dicho antes las viviendas en euskadi por cuestiones que quizá requieran una reflexión pues tienen un precio elevado

entre territorios pero generalmente tanto en el régimen de alquiler como en la compra son viviendas que tienen un alto precio por tanto

reducir la brecha salarial también lo ha comentado el señor estarrona está recogido en nuestra enmienda transaccional romper con esa brecha salarial y especialmente poner énfasis

y por otro lado lógicamente aplicar nuevas políticas de vivienda que faciliten ese acceso a las mismas en esta cuestión sí me gustaría lógicamente el objetivo debiera de ser la reducción de ese precio no suele ser fácil que a través de las políticas del gobierno se pueda incidir directamente en la reducción de ese precio es más quizá

pudieran provocar el efecto contrario es decir a medida que se suben las cuantías de las ayudas para que esos jóvenes puedan emanciparse el mercado también puede optar

esas políticas tengan que ser redirigidas tengan que ser ajustadas para tener una política propia un parque de vivienda propio ajustado a esas necesidades de los jóvenes para eso lógicamente hay que incrementar el número

es sencillo especialmente porque el número de promociones que tenemos planteadas o que tiene planteadas el departamento de vivienda es la que es y que por otra parte

viviendas deshabitadas pues no es quizá en las condiciones que este gobierno puedan permitirse para captar el mayor número o todo el número de viviendas

deseables para aplicar estos programas por tanto quizá la reflexión también tenga que venir por la vía de la búsqueda de nuevos modelos convivencia entre los jóvenes nuevos modelos que permitan que esos jóvenes puedan emanciparse vamos a decir que al margen de lo que tradicionalmente

emancipación no solo en este país sino la mayoría de los países de la unión europea lógicamente hay una tarea pendiente que es el desarrollo de las cuestiones pendientes de la ley de vivienda cuestiones que también se están trabajando pero que existen o que tienen

jurídicas que espero que este gobierno consiga salvarlas a la mayor brevedad posible porque sin duda en el desarrollo esa ley de vivienda también hay una buena herramienta para aplicar

de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes lo ha dicho también el señor estarrona y nosotros a través de esta enmienda transaccional de alguna manera damos

quien detecta que el programa gaztelagun no ha tenido el efecto deseado o el efecto previsto en un inicio en su puesta

hay que modificarlo hay que adaptarlo hay que hacerlo atractivo o más que hacerlo atractivo hay que hacerlo por tanto el gobierno tal y como se comentó durante la semana pasada en un debate que se produjo en la comisión

y posibilitar que sea más atractivo y que los parámetros las condiciones que rigen ese programa sean las más adecuadas captar el máximo de jóvenes posibles por tanto creo que tenemos unas buenas mimbres para ir redireccionando las políticas públicas de este gobierno a mí no me cabe duda que ambos departamentos los dos departamentos que están implicados vamos a decir que en esta enmienda transaccional no se van a poner manos a la obra desde ya sino que llevan tiempo

detectar esas deficiencias intentando adaptar los programas que ya tienen en marcha para que sean lo más eficientes posibles y lógicamente como decía al principio

hace falta un compromiso social de todos los agentes implicados y de agentes que aunque no están implicados también pueden aportar a ofrecer un mejor futuro a nuestros y nuestras jóvenes pero sin duda alguna

que la cuestión no va a ser nada fácil lamentablemente creo que ninguno de los aquí presentes tenemos esa fórmula mágica que posibilite que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades u oportunidades inmediatas para revertir esta situación

por tanto apelo a esa colaboración no solo de los grupos representados en esta cámara sino de toda la sociedad vasca por apostar por nuestros jóvenes porque dependiendo
del futuro de ellos también tendremos un futuro nosotros eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

parece ser que hay unanimidad entre todos los grupos en el primer punto del orden del día de esta mañana y es algo que lejos de llevarnos a la alegría tiene que llevarnos a la preocupación

de la situación de la juventud es negativo es malo a estas alturas de la legislatura no puede ser por otra cosa sino porque las políticas que se han dirigido desde su gobierno hacia este colectivo de ciudadanos vascos no ha sido el correcto no se ha ejecutado bien o no estaba bien hecho el diseño de esas necesidades de los jóvenes

de la cartera de empleo y juventud a día de hoy se ha reducido la población de jóvenes vascos desempleados exclusivamente en unos doscero dosquinientos jóvenes

del total de jóvenes que había cuando usted llegó al gobierno y cuando usted se hizo cargo de ese diseño de políticas de juventud usted en aquella presentación nos hablaba de grandes números de miles de jóvenes que iban a tener la primera oportunidad en el empleo

se ha conseguido correctamente y ese es desde mi humilde análisis el gran problema por el cual los jóvenes no pueden emanciparse

el problema por el que los jóvenes no pueden emanciparse no es porque el programa de gaztelagun no funcione que también

no solamente nuestros jóvenes como os he dicho aquí son muy mayores a la hora de emanciparse si los comparamos con el resto

hoy hace treinta hace cuarenta y hace cincuenta años en determinadas zonas de europa los jóvenes

a eso de los dieciocho diecinueve años y eso en españa no ha ocurrido nunca

las diferencias y eso nos debe al menos llevar a la preocupación

a crear en la empresa privada solamente han alcanzado entiendo que se van moviendo en las personas y que son más los afectados que el número neto

el paro juvenil dobla a la media de paro general y eso es una situación muy preocupante y eso es algo en lo que están de acuerdo los grupos de la oposición supongo que el señor portavoz

de que termine yo mi intervención comparte ese diagnóstico y lo ha compartido el proponente y lo comparten que es lo realmente importante los dos grupos que sustentan al gobierno digo que es lo realmente importante porque hace diez días

y le cayó un suspenso al consejero que hoy no está presente para oír hablar de este tema quizá porque tenga cosas más importantes que hacer

nos dice la portavoz del partido nacionalista vasco que eso no sirve de nada que para los jóvenes no sirve de nada pues mire usted sí ese suspenso ha supuesto un giro radical en la posición que ustedes tenían hace diez días

las cosas tan mal que las críticas eran exageradas resulta que la realidad es que hoy van a suscribir una enmienda con los grupos de la oposición que el grupo popular

para que se cambie ese diagnóstico a mí me hubiera gustado más que el señor arriola

subiera aquí a darnos las explicaciones o que corriera a solicitar su comparecencia en la comisión para dar una explicación de qué es lo que está pasando

el proponente de esta iniciativa hacía referencia que es de un total de cincuenta y cuatro millónes que acabe el año y no llegue a una ejecución de un millón de euros supone

que el diagnóstico estaba mal hecho y esa cantidad no era necesaria que puede ser una de las razones porque el consejero no nos ha dado ninguna y sus portavoces tampoco nos lo han explicado que la convocatoria estaba garrafalmente mal dirigida y mal hecha y los requisitos no son

o que quizá hay otros muchos programas desde otras instituciones que quieren cubrir ese mismo

todavía recuerdo aquello de que una competencia una administración y en estos asuntos se pegan todas las administraciones por sacar sus propios programas de ayudas y eso al final nos lleva a un fracaso estrepitoso ni siquiera un millón de los veintidós coma cinco previstos es un fracaso para todos

muy especialmente para el departamento de vivienda el único éxito de ese programa es el que tiene el señor azpiazu que le va a permitir ahorrarse veintiuno millónes de euros en las cuentas de este ejercicio

no creo que esta sea la mejor o la más efectiva de las herramientas la mejor

tiene bajo su departamento bajo sus dominios que es crear empleo para los jóvenes que los jóvenes no se vayan que los jóvenes puedan emanciparse

individual en el país vasco no tener que marcharse fuera y en unas condiciones económicas que les permita la emancipación de los hogares familiares muchas gracias eskerrik asko

ciertas afirmaciones en el hemiciclo pues se van generando estados de opinión y se van reafirmando algunas ideas y

la pirámide poblacional no es necesariamente negativa es la primera vez realmente que nos enfrentamos a la posibilidad de disfrutar vidas enteras y de que convivan

que esto nos obliga a pensar y responder a preguntas muy concretas que permitan que se puedan desarrollar los proyectos de vida y de felicidad y por poner

que las personas jóvenes tengan hijos per se lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que esas personas jóvenes decidan si quieren tener hijos si no y cuando tengan hijos si así lo deciden cuántos hijos o hijas desean tener eso es un poco el cambio de paradigma al que nos enfrentamos

decía eso que seguramente no se haría pero usted ha admitido que es un paso adelante yo creo y lo único que voy a hacer ya para terminar mi intervención es poner en valor

porque decir que el parlamento considera imprescindible dar un salto

me parece que eso simplemente como intencionalidad política tiene potencia y tiene

el suficiente valor hemos dicho que en el plan estratégico de empleo

establecer a partir de este acuerdo dentro de sus objetivos principales una línea de actuación concreta

también se va a abrir una línea específica en el mismo ya que hasta ahora no está recogida para aquellas mujeres

a esa brecha salarial y luego en cuanto a las políticas de vivienda además del mencionado y fracasado programa gaztelagun que requiere realmente una reformulación a fondo

destinar más recursos también al departamento de vivienda ya que en las últimas décadas el presupuesto destinado a vivienda en la comunidad autónoma del país vasco se ha visto reducido en un treinta por ciento por lo tanto creemos que hay que darle la vuelta a esa situación decimos que la política de vivienda sea

todavía queda por desarrollar algunos puntos muy importantes de la misma

urgente del parque público de vivienda de alquiler y mayor adquisición por parte del gobierno de viviendas de alquiler limitado para gestionarlas a través de alokabide e incluso décimos que se aplique un sistema de baremación adecuado para garantizar dicho

poner en valor otra vez las nuevas tipologías de vivienda que creo que

es verdad que son cuestiones que hay que empezar a valorar a trabajar y a poner en marcha ya sea mediante proyectos piloto ya sea mediante proyectos en marcha como los que ya he comentado

señor estarrona no me coja el rábano por las ramas

la pirámide que tenemos actualmente claro que arroja oportunidades y claro que también tiene ventajas pero también tenemos que reconocer que presenta una serie de dificultades a las que tenemos que hacer

ni la nada claro que tiene cosas positivas yo incidía en las negativas porque en relación a lo que hoy estábamos debatiendo entendía que era relevante

con usted hoy claro que se da un salto cualitativo en cuanto a la puesta en marcha de políticas que favorezcan la emancipación de

que hemos firmado tanto los dos grupos que sustentamos el gobierno como el grupo eh bildu creo que deben de ponerse en valor por supuesto que sí yo creo que en este sentido

buscar ese acuerdo desde un inicio lo hemos conseguido y creo que es algo que hay que poner en valor y porque además creo que esa transaccional tiene propuestas que tienen sustancia y que tienen su valor y que probablemente nos vayan a permitir desde el gobierno y tanto desde este parlamento

las políticas que ya están en marcha y creo que eso representa o pone de manifiesto una actitud positiva y proactiva por parte de los tres grupos y también

sus propuestas por motivos técnicos no las hemos podido debatir o incorporar a esta transaccional pero creo considero que demuestran

positiva una actitud proactiva en la mejora de otros pues probablemente no pueda decir lo mismo y se ha mencionado

eso sí que hubiera sido un fracaso y también hay que poner en valor que este gobierno los ha puesto en marcha los ha diseñado con mayor o menor acierto

bueno tiempo hay para adaptarlo tiempo hay para adecuarse a la realidad aquí se hablaba de un error en el diagnóstico

es un programa que se puso en marcha el uno de enero de este mismo año démosle también tiempo al tiempo veamos cómo se

veamos si las nuevas medidas la adecuación de esos programas permiten que tengan un mayor éxito

hay un número importante de millónes de euros dentro de ese presupuesto que ya son una declaración de intenciones y una apuesta por los jóvenes de este país

pongámoslo en valor que lógicamente hay que mejorarlo yo no lo voy a poner en duda qué probablemente a medida que lo vayamos adaptando incremente el número de jóvenes que se adhieran a esos programas probablemente también pero aquí yo creo que estamos para aportar

de venir a este parlamento a esta cámara a debatir las propuestas del partido popular al respecto de los jóvenes

y además de críticas tenemos por su parte alguna propuesta en la que poder
mejorar todos los programas que ya están en marcha gracias eskerrik asko andueza jauna gurrutxaga

tendremos unanimidad gracias a que el partido popular va a votar a favor al primer punto que es el que dice que la situación es mala y

no hemos oído ni una sola propuesta que puede hacer que la situación de la juventud vaya

que propone el partido popular en este aspecto más que saber que el gobierno lo hace fatal en

de ver no hay ninguna propuesta y el suspenso que la semana pasada se le quiso dar yo estoy segura que los jóvenes no nos ha hecho ningún favor

ninguna acción para mejorar nuestra situación por lo que no veo

cuál es la mejora que se ha conseguido desde los grupos que sustentábamos al gobierno creíamos que también había que cambiar esas condiciones y creíamos que para mejorar esas ayudas y para que llegaran a más jóvenes había que modificarles por lo que todos en eso estábamos de acuerdo ahora se le quiso dar un suspenso y así los hicisteis pero creo que eso no hizo ningún favor

gracias señora presidenta el hecho de calificar de suspenso

una política concreta del departamento de vivienda el programa en concreto de gaztelagun no es

se intenta afear la labor del gobierno cuando se ha equivocado quizá a usted eso le parezca una labor inútil pero es que esa es la labor de la oposición controlar la acción del gobierno ah no es controlar la acción del gobierno la labor de la oposición caray pues ya me sorprende me sorprende casi tanto como el señor andueza que dice que poner muchos millónes en una partida

con las partidas del presupuesto nuevo que le están haciendo porque igual ponen muchos millónes en una partida para hacer una declaración de intenciones y luego llegar a ejecutar un dos

de los consejeros socialistas porque igual están llenas de declaraciones de intenciones y ese dinero lo necesitan ustedes en otros departamentos para hacer política de verdad no política

creo que me he equivocado al calificar la labor del gobierno en este aspecto en concreto el señor arriola como de fracaso

o varios le podía decir rotundo fracaso estrepitoso

vergonzoso o bochornoso fracaso usted siga insistiendo en que poner millónes y millónes de euros para cubrir una necesidad de los jóvenes vascos en una partida cuéntenos que es una declaración de intenciones

si esa es la política que quieren hacer yo de verdad mire le voy a dar una iniciativa ya que dicen que desde el grupo popular no proponemos iniciativas

que inmediatamente si no lo ha hecho ya venga a la comisión correspondiente nos dé las explicaciones de cuales han sido los errores para el rotundo y vergonzoso fracaso de la ejecución del programa gaztelagun

presupuestaria que tenía asignada en el presupuesto vigente dígale por favor que venga que ese diagnóstico que usted ha dicho y la señora castelo nos dijo el otro día en la comisión que ya se ha hecho

que venga y que nos diga dónde están los errores que nos diga cuales son las nuevas propuestas y nosotros trataremos con nuestra buena voluntad de ayudarle a mejorar

no le tendremos que decir que ha vuelto a suspender y no le tendremos que decir

y si es caso y los resultados son buenos le daremos la enhorabuena como lo hemos hecho muchas veces cuando el gobierno acierta y en este caso desde luego ninguno de los dos departamentos

ni el de vivienda está acertando con el programa que tienen los jóvenes para conseguir emancipándose y los datos son objetivos

buenos días muchas gracias presidenta lehendakari consejero señorías bien seré breve puesto que

todos los grupos parlamentarios en relación con el apoyo

tanto al señor becerra a la señora pinedo a la señora sánchez al señor urrutia

al acoger esta necesidad que hemos identificado en esta legislatura en estos dos últimos años hemos vivido cosas relevantes en torno a la economía social lo estamos haciendo
en este momento en la tramitación isiltasuna mesedez gracias presidenta

de la ley de cooperativas de euskadi es un buen momento para hacer

la actividad legislativa trata en relación con uno de los elementos de la economía social tan relevante en nuestro país como son las cooperativas y aprovechar a que todo eso pueda formar parte de una actuación estratégica

al conjunto del sector de la economía social del país vasco efectivamente son necesidades y

en estos dos últimos años hubo un debate importante en la comisión

en relación con una comunicación del gobierno sobre la economía social comisión en junio del dos mil dieciocho donde tuvieron lugar donde se presentaron y se aprobaron una serie

de propuestas de resolución declarando además como conceptos generales a la economía social como un modelo enraizado en nuestro pueblo en nuestra cultura y que es también expresión significativa y eficiente de diferentes

de generación de empleo de generación industrial económica

crisis que se recogen de forma adecuada en ese concepto

bien conocemos y que bien conocen quienes fomentan la economía social y quienes se mueven

económica y también había importantes resoluciones en relación con instar al gobierno a que incluya

y dotación económica para el impulso de emprendimientos basados en valores de naturaleza colectiva y social

ese marco de debate que tuvimos en la comisión de trabajo pues ese debate monográfico la aprobación de esas propuestas de resolución eran un buen

para otras cuestiones que puede seguir haciendo

y décimos que había habido también elementos importantes durante estos dos últimos años tenemos que recordar cómo en bilbao también en dos mil dieciocho se reunió el foro global de economía social o sea una entidad que reúne a experiencias de economía social de todas partes del mundo

hubo un compromiso bien claro en lo que es la resolución final del foro global que lo celebramos aquí en relación con la economía social

con esos valores en relación con esos principios que tienen que ver con una forma de hacer trabajo de generar empleo de generar crecimiento económico y que son viables que son eficientes que crean valor social beneficios económicas y que

su competitividad radica en el impacto social generado por su actividad

esa actividad entendemos que ha habido momentos relevantes la aprobación de esta ley que estamos llevando a cabo en el parlamento vasco sobre una forma de economía social como son las cooperativas ese foro global ese debate en la comisión sobre economía social yo

la moción llega bastante tiempo después pero yo creo que es un buen momento en este

con una cuestión que le exigimos al gobierno o que le pedimos al gobierno desde este parlamento y que es ese plan estratégico esa estrategia de economía social

como creación de empleo como posibilidad de creación de empleo de calidad como fórmulas de creación de empresa como estímulo a la economía social tenemos que reconocer que las empresas de economía social

como la seña de identidad de las mismas en nuestra tierra pero es muy importante el valor de las sociedades laborales es muy importante el valor de las empresas

de asociaciones y de fundaciones que tienen actividad económica que se mueven

entendemos que hay mucho campo de maniobra para qué para eso para generar empleo para general empleo de calidad y para generar también crecimiento económico

es claro también tiene como dos partes uno en relación con el plan estratégico y otro con el repaso a lo que han sido las resoluciones del debate

y la iniciativa que hemos firmado todos los grupos parlamentarios habla que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que a partir de la aprobación de esta iniciativa los trabajos dirigidos a elaborar un plan estratégico de economía de carácter interdepartamental será una buena aportación efectivamente al ser un plan estratégico de economía social

sino que involucra al conjunto de los departamentos del gobierno vasco está bien claro que el departamento

de competitividad el departamento de hacienda otros muchos departamentos

la economía social se dispersa en muchos ámbitos eso lo estamos viendo también en la propia ley de cooperativas porque hablamos de transporte hablamos de vivienda hablamos

que pueden ser analizadas eso en las cooperativas pero en el conjunto de la economía social con un carácter estratégico

eso es importante efectivamente reconocemos la labor del gobierno vasco en relación con el impulso a la economía social en planes en programas de ayudas concretos yo creo que podemos hacer un esfuerzo

actuaciones específicas poder ir más allá con un plan estratégico de economía social en ese sentido englobando lo que ya se hace y aportando desde luego

el segundo punto el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que la citada estrategia de economía social se elabore con la participación directa y activa de todos los agentes de la economía social de modo que responda a las demandas necesidades de este sector de la economía social todos sabemos lo activos lo comprometidos que son con sus principios

las asociaciones las federaciones las confederaciones que engloban a cooperativistas a sociedades laborales

todos tenemos en la cabeza a confecop

asociaciones importantes con las que hay que tener en cuenta y con las que hay que acordar y con las que hay que trabajar esta estrategia vasca de economía social

o sea que en ese sentido es un factor positivo añadido y facilitador de lo que tiene que ser esa estrategia y por último le instamos y le pedimos al gobierno vasco

la interpelación algo la señora consejera pero que en un plazo de tres meses

un informe en relación con el grado de cumplimiento y medidas adoptadas a tal fin de las resoluciones aprobadas el cuatro de junio del dos mil dieciocho en el marco del debate parlamentario

que fueron muchas las propuestas de resolución algunas coincidentes algunas un tanto repetitivas

un informe de estado de situación de esas

se hayan podido ir implementando acciones o identificando cuestiones

donde hemos trabajado sobre economía social y lo queremos seguir haciendo con esta estrategia que pedimos que elabore el gobierno muchas gracias

no es tanto si queremos economía social que en eso hay un acuerdo general sino cuál es el papel de la economía social para qué queremos la economía social si se me permite la expresión porque no todos los agentes que se dicen de la economía social se están comportando en la realidad

y porque la economía social en última instancia es una economía transformadora una economía que busca cambiar el paradigma de la sociedad capitalista dónde dónde la economía está en el centro y donde lo importante es el crecimiento y la rentabilidad financiera mientras que en la economía social

sino que lo ocupa el desarrollo económico y cuando décimos que en la economía social otra forma de hacer empresa es posible ahí es donde se ve cuándo

si defendemos un modelo más humanista o más social de empresa es cierto que tenemos que tener en cuenta el empleo

de la inserción de personas en riesgo de exclusión o con diversidad o psíquica o de la mano de la conciliación de la vida personal y familiar cuando la economía social estamos hablando de poner en marcha un proyecto empresarial también pondremos a la par el desarrollo local donde se insertará ese proyecto y el arraigo de ese proyecto en la sociedad ahora que está tan de moda hablar del arraigo de las empresas o el desarraigo de las empresas capitalistas y cuando hablamos de una gestión empresarial eficiente en la economía social tendremos que hablar también

o de una gestión más democrática y participativa y por eso porque en la economía social no siempre está siendo así por eso necesitamos una estrategia

orientar los recursos escasos de los que dispone el gobierno vasco esos resultados en los cuales tenemos una gran disparidad

sociedades anónimas laborales fundaciones asociaciones sin ánimo de lucro o redes colaborativas necesitamos evaluar en detalle

esas empresas de la economía social sino cuál es su resultado social cuáles son sus resultados en materia de empleo pero también de integración de desarrollo humano

de las personas que integran esos proyectos por lo tanto nuestro grupo apoya la enmienda transaccional a la que hemos llegado donde

orientar los recursos y evaluar lo que se ha hecho hasta la fecha para que lo que busquemos sea un modelo que nos permita llegar a una sociedad más justa más sostenible más
solidaria y más democrática que al fin y al cabo creo que es el objetivo que buscamos todos los grupos en esta cámara eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna

en aquel debate de junio del dos mil dieciocho mostramos con claridad nuestro apoyo a la economía social como hoy se ha dicho pero a la economía social en todas sus formas y mostramos también nuestro pesar por la poca ambición de este gobierno y la falta de una estrategia y definida por parte del gobierno respecto a la economía social y los valores que esta representa reclamamos al gobierno en aquel debate que marcara el rumbo que marcara la estrategia a seguir por los diferentes agentes porque lo que

diferentes áreas del gobierno e incluso de diferentes agentes

en relación a la economía social porque es necesario una coherencia entre las diferentes políticas a seguir para reforzar como todos y todas hemos hecho más de una vez la economía social

lo que supone la economía social en nuestro país porque si consideramos la economía social como un eje vertebrador del futuro de nuestro país este gobierno debe fijar una estrategia clara una estrategia a seguir estrategia debe contener acciones pues para llevar a cabo diferentes líneas de trabajo

del conocimiento de las diferentes figuras de la economía social de la intercooperación de tantas y tantas cosas que dijimos en aquel debate porque la economía social está viva y porque la economía social forma parte del día a día de nuestra sociedad cuando el señor barrio presentó en noviembre del año pasado la moción que hoy debatimos teníamos muy reciente el debate

que habíamos tenido en junio como bien ha indicado en comisión

que el gobierno diera cumplimiento a las resoluciones aprobadas en aquella comisión

en aquellas propuestas que buscaban impulsar la creación de empleo de calidad

el reconocimiento de la economía social como agente social de primer orden y la materialización de la representación de este en los órganos de decisión aquella fue nuestra solicitud

tamalez ez dute ireki nahi podemos hablar de planes de actuación como hacía el gobierno podemos hablar de pactos como hacía el señor barrio

o de estrategias como hablábamos nosotros desde eh bildu en el debate de la comisión de junio todos y cada uno de ellos pueden albergar buenas intenciones

en su sentido más amplio no avanzaríamos si no se reconoce a los agentes de la economía social como agentes económicos de primer orden

en la larga lista de documentos sobre la economía social que se han hecho en nuestro país si no tenemos claro

sean tratados como lo que son insisto agentes de primer orden eta hori da gaur hemen eskatu nahi duguna

handiak finkatuz y por eso hemos firmado esta transaccional

que ha sido relativamente fácil de trabajar sobre ella le agradezco las aportaciones que hicimos desde eh bildu están

no solo que sepamos cuál es el grado de cumplimiento de aquellas propuestas de resolución si no qué

a esas propuestas de resolución le han dado tres meses nosotros

alguien ha sido más benévolo y le ha dado un mes más aprovéchelos

para que la economía social sea de verdad reconocida en nuestro país porque es un agente económico importante en el día a día de muchos trabajadores y trabajadoras de este país eskerrik asko

muchas gracias presidenta hoy debatimos una moción

por un pacto vasco en la economía social consecuencia de una interpelación que se presentó ya en el pleno de este parlamento el veintitrés de noviembre del año pasado esta moción se iba a debatir en el pleno del doce de diciembre

casi un año después pero durante este tiempo se ha seguido avanzando en el trabajo realizado desde el gobierno en materia de economía social la trayectoria y el trabajo desarrollado en la comunidad autónoma de euskadi en economía es de los más avanzados en españa y en europa lo demuestra su fortaleza y la tradición de colaboración institucional con el sector desde hace

por lo que llevamos muchos años invirtiendo esfuerzos y medios económicos para conseguirlo

con los planes de actuación de la dirección de economía social dos mil diecisiete dos mil veinte que se presentaron en este parlamento en el primer semestre del dos mil dieciocho

más representativos de la economía social a la que se añadieron cincuenta y ocho aportaciones desde todos los grupos

en un monográfico de economía social el cuatro de junio del año pasado en este parlamento hay

dos mil diecisiete dos mil veinte que junto a la iniciativa parlamentaria sobre el modelo vasco

completan las actuaciones de economía social en euskadi y se han seguido haciendo cosas desde entonces a su vez los objetivos sobre creación de empresas y empleos

tal como manifestó en su intervención la consejera de trabajo y justicia en el pleno del veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho el departamento de trabajo

haciendo y sigue impulsando la creación y consolidación de empresas de economía social pero estas acceden a todas las medidas de apoyo del conjunto del gobierno es decir las empresas y entidades de economía social vasca acceden a todas las líneas de ayudas del conjunto del gobierno

hay seis proyectos liderados por la dirección de economía social que tienen por objeto un análisis exhaustivo y completo de la economía social vasca todos ellos concluirán en el dos mil diecinueve y se darán cuenta de sus resultados como son el proyecto pilar social europeo sobre transformación social

el proyecto medioambiental relativo para la puesta en valor de la economía social y transformación medioambiental donde están participando

proyectos herramientas de transformación económico empresarial social medioambiental y personas y organizaciones donde están apoyando las tres universidades y participan lks y proyectos e indicadores

más relevantes de la economía social vasca donde participan también las tres universidades del país vasco y los proyectos anteriormente mencionados

para la puesta en valor de estas considerando la economía social como elemento de transformación de las sociedades en cuatro ejes la transformación económico empresarial

la transformación medioambiental y la transformación de personas y organizaciones es la primera vez que contamos con un relato similar en euskadi y se presentará el día diecinueve de noviembre en la sede del gobierno vasco

por último el proyecto currículum educativo vasco sobre el análisis y creación de material didáctico para la formación de unidades didácticas de economía social sobre cooperativismo sociedades laborales donde está participando la federación de ikastolas de euskadi se va a llevar a cabo una campaña de comunicación para la difusión de economía social en euskadi durante el año dos mil veinte

de los proyectos fundamentales para el próximo ejercicio es el emprendimiento en la economía social que se va a desarrollar con los agentes más importantes del sector se va a contar también con estructuras comarcales como ezkerraldea u oarsoaldea

a las de más alto desempleo así como centros tecnológicos y entidades financieras en este aspecto se están preparando pliegos para realizar un concurso para la contratación

la ponencia para la aprobación de una nueva ley de cooperativas que será aprobada

en este parlamento todo esto supone que se está consolidando una verdadera estrategia vasca de economía social con una amplia participación de todos los agentes

actuaciones están y han estado encaminadas a preparar el terreno para plantear el plan estratégico de economía social

donde participarían todas las consejerías del gobierno con materia en esta cuestión y como se ha estado avanzando en los últimos años en esta línea no veíamos ningún inconveniente

con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta cámara y agradezco a todos los grupos de la misma el esfuerzo que hemos

llegar a un acuerdo unánime en una materia tan

la economía social y en esta enmienda transaccional se recoge la necesidad de realización de ese plan estratégico de economía social de euskadi que va a tener un carácter interdepartamental y también la necesidad de implementar los recursos

para su desarrollo y aunque esos trabajos como ya he indicado en mi intervención ya se han iniciado por parte del departamento de trabajo del gobierno vasco sí que veíamos importante que se recogiera en este punto y luego en el punto segundo hace referencia

de la economía social y este punto también lo veíamos lógico porque además se ha venido haciendo así y se debe de seguir haciendo así y también nos parecía correcto que se inste al departamento de trabajo y justicia del gobierno vasco que en el plazo

para saber cuál es el grado de cumplimiento de las diferentes resoluciones aprobadas en el monográfico del cuatro de junio del año pasado

en el ámbito de la economía social y en eso todos los grupos parlamentarios de esta cámara estamos de acuerdo nada más y muchas gracias eskerrik asko

legebiltzarkideok hoy traemos a debate una proposición de ley de memoria histórica elaborada

del franquismo que además nos acompaña

para la recuperación de la memoria histórica asociaciones de víctimas de la dictadura y del golpe fascista de mil novecientos treinta y seis

y sindicales relevantes a la hora de tratar esta cuestión por el hecho de que también fueron víctimas colectivas de aquel levantamiento militar y de aquella dictadura

que está teniendo un papel fundamental en nuestra comunidad para la recuperación de la memoria histórica y para la búsqueda de los principios de memoria verdad

de no repetición que deben regir las acciones las políticas pero también la legislación en materia de memoria histórica

se trata por lo tanto en nuestra opinión de un proponente con una autoridad moral indiscutible para esta cuestión un proponente de la sociedad civil al que se le debe dar una oportunidad y al que desde luego no se puede ignorar desde las instituciones no se les puede ignorar desde este parlamento

y en esta cuestión concreta la plataforma no ha tenido el trato más adecuado por parte del gobierno vasco

esa es la única razón por la que hoy estamos aquí de esta manera y no de otra manera posible esa es la razón por la que hoy dos grupos parlamentarios traemos una proposición de ley que no es nuestra que hacemos nuestra pero es la proposición

importante que se ha visto abocada a buscar esta fórmula como única oportunidad real de que tengamos en esta legislatura una ley de memoria histórica en euskadi el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco no querían una ley de memoria histórica porque no la veían necesaria

durante mucho tiempo en febrero del año dos mil dieciocho debatimos sobre esta cuestión después de que previamente este parlamento ya hubiera rechazado una iniciativa que trajo

en esta cámara después también de que este parlamento rechazase aquella proposición de ley sobre reparación jurídica de las víctimas de la dictadura que trajimos

y acordamos una proposición no de ley partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi eh bildu y elkarrekin podemos en la que instábamos a gogora a realizar un informe sobre potencialidades y carencias en las políticas de memoria en euskadi

elkarrekin podemos intentó que en aquel acuerdo se recogiese expresamente que el parlamento vasco consideraba necesaria una ley de memoria histórica

nosotros ya teníamos clara la cuestión y defendíamos que era necesaria

que alcanzamos fue que dependiendo del informe se acometiera la ley en su caso

de en su caso porque el partido nacionalista vasco la creía en aquel momento innecesaria el informe definitivo encargado por gogora a unos expertos llegó en noviembre del año pasado

tras conocer el informe la misma opinión no era necesaria una ley de memoria

compareció en este parlamento tres meses después de conocerse este informe en el mes de febrero de este mismo año dos mil diecinueve

o bien el parlamento deberían impulsar una ley de memoria

la elaboración de una ley de memoria y nos preguntaron a los grupos si estábamos dispuestos a impulsarla lamentablemente el principal partido en el gobierno el partido nacionalista vasco

que ellos consideraban innecesaria una ley de memoria histórica

el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco hasta el pasado mes de julio esta es la única razón por la que en aquella comparecencia la plataforma explicó

una iniciativa legislativa popular para que se debatiera y pudiera ser aprobada una ley de memoria el partido nacionalista vasco

una ley que él mismo tildaba de innecesaria y el partido socialista

en nuestra opinión estaba atrapado en un gobierno que no la pensaba ni impulsar ni desarrollar por eso la plataforma nos dijo a todos los grupos en el mes de febrero ellos la ley porque veían que era la única opción para que debatiéramos

en esta legislatura el partido nacionalista vasco conocía esto el partido socialista conocía esto y el gobierno vasco también conocía esto los partidos del gobierno conocían perfectamente desde febrero que la plataforma traería una iniciativa

el gobierno lo conocía perfectamente y en ningún momento entre febrero y julio nadie dijo que cambiase de opinión el gobierno vasco mantuvo esa misma posición tras aquella comparecencia

en este parlamento en el mes de julio les dijo a los periodistas que ellos ya estaban elaborando un borrador del que nunca nadie había oído hablar

los grupos parlamentarios no habían oído hablar de él

y ni tan siquiera había oído hablar de él uno de los socios del gobierno el partido socialista en nuestra opinión se trataba de una operación clara

y poder tal vez tener un argumento para rechazarla el gobierno creemos que no estaba dispuesto a que el parlamento aprobase una iniciativa

sobre una cuestión sobre la que no tenían previsto legislar y que había sido tildada de innecesaria por el partido nacionalista vasco en una comisión parlamento ya dije en una ocasión en esta cámara que ni el acuerdo de gobierno ni el programa legislativo presentado por el gobierno para esta legislatura

no estaba por lo tanto entre los planes del gobierno impulsar legislación en relación a la memoria histórica en esta legislatura y repito lo que dije en otra ocasión

no hemos criticado nunca esto porque el gobierno no es el único actor con capacidad para impulsar legislación y por lo tanto lo que hacemos y lo hacemos nuevamente hoy es poner en valor que tenemos una cámara legislativa un parlamento

que tenemos capacidad para impulsar legislación sobre memoria histórica y donde hay una sociedad civil que tiene también herramientas para que este parlamento legisle

de plantear legislación sobre memoria histórica sino que cuando bien grupos de la oposición o como en este caso

una proposición de ley de memoria histórica integral ustedes la rechacen y que no sea la primera vez que la rechacen

en esta cuestión no es aceptable que la rechacen

que es sensible para los diferentes grupos de esta cámara en un país

brutal y terrorífica nosotros pensamos aunque desde luego vamos a pedirles

la orientación del voto pero si no es así pensamos que van a cometer un tercer error como el que cometieron el día

aquella proposición para la reparación jurídica de las víctimas de la dictadura y como el error que en nuestra opinión cometieron el día que rechazaron

del señor arzuaga porque de la aprobación

depende que tengamos una ley de memoria histórica en esta legislatura lo que votemos hoy permitirá o no que la ley llegue a tiempo

hoy vamos a votar tener o no tener una ley de memoria histórica en esta legislatura

ustedes saben que nuestra coalición se ha manifestado de manera reiterativa sobre la necesidad de discutir y aprobar una ley de memoria histórica para nuestra comunidad porque consideramos necesario contar con una legislación más completa que la existente en estos momentos pero sobre todo porque se debe ordenar y dotar

en nuestra comunidad la legislación estatal fundamentalmente

además de ser mejorada y que ha sido vaciada durante mucho tiempo tiene que ser aterrizada en nuestra comunidad dotándonos de una legislación específica

y oriente las políticas y las acciones para la memoria histórica

y esto es muy importante que estas estén al albur de la voluntad del gobierno de turno o de la mayor o menor dedicación y empeño del instituto gogora

ni a la legislación existente en esta comunidad hasta la fecha de la cual mi partido político ha participado y de una manera determinante además

a las acciones que pueda llevar realizando el instituto gogora desde su creación es simplemente decir que necesitamos esa ley para garantizar

la política de memoria histórica sin un marco

pero creo que tenemos que compartir que necesitamos ese marco los pasos dados hasta el momento tanto en el ámbito competencia del estado como los dados en nuestra comunidad

porque seguimos sin contar con los instrumentos legislativos necesarios para desarrollar nuestra memoria en base a esos principios de verdad memoria justicia reparación

y es necesario en nuestra opinión legislar en materia de memoria histórica porque vivimos en un país

un cruento levantamiento golpe armado contra la realidad democrática que

una dictadura y que acabó con todo vestigio democrático provocando cientos de miles de víctimas y violaciones de derechos humanos y políticos un régimen que no acabó de una manera abrupta y que por lo tanto dejó muchas tareas pendientes y esta es una de ellas si cuatro décadas después del final de esa dictadura no ha sido posible cerrar las heridas de las que tanto se habla es entre otras cosas porque las leyes del nuevo sistema

ni las más convenientes en muchos casos para asegurar los principios de los que hemos hablado y por eso tenemos una importante tarea pendiente pero estamos a tiempo y nos toca abordar ya una ley de memoria histórica en euskadi y por eso pensamos que debemos dar nuestro respaldo a esta iniciativa que en realidad trae la plataforma contra los crímenes del franquismo debemos dar nuestro respaldo a que se tramite esta proposición de ley

en nuestra opinión tener el respaldo de todos los grupos o al menos de los grupos que apoyan al gobierno en la votación de hoy para después modificarla sí la proposición de ley es sin lugar a dudas como todo en esta vida mejorable y le faltarán cosas necesarias seguro y también

excesos los cuales si alguien piensa así podrán ser limados y debatidos en el proceso de enmiendas hoy no aprobamos o rechazamos el contenido de esa ley sino que vamos a aprobar o rechazar tramitar la proposición de ley por lo que la cuestión es si creemos oportuno abordar ya una ley de memoria histórica o no para mi grupo esa es la cuestión fundamental hoy y sobre todo si nos parece importante que esta ley

o no si hoy votamos a favor tendremos una ley de memoria histórica en esta legislatura si hoy este parlamento rechaza esta proposición de ley no la vamos a tener esta legislatura votar en contra supone que en el mejor de los casos nos vamos a condenar a no tener una ley

hasta dentro de varios años en la siguiente legislatura y veremos qué pasa por eso yo hoy sobre todo lo que quiero aquí es sumarme a la petición que hizo ayer la propia plataforma petición

de euskadi petición a la reflexión petición a que le den una oportunidad petición

de los grupos en esta cámara sea el mismo que aquel día que acordamos una proposición no de ley creo que no deberían de tener miedo a que se tome

creo que las cuestiones de contenido que pueden preocupar a los grupos que apoyan al gobierno las podemos abordar en el proceso de enmiendas creo que la correlación de fuerzas en esta cámara

ningún tipo de miedo sobre esta cuestión estoy absolutamente convencido de que si hoy le damos paso a esta iniciativa vamos a ser capaces de que el contenido final

se inicia va a tener el respaldo mayoritario de la cámara y desde luego mi grupo en esta cuestión va a ser muy serio y muy pragmático

a la tramitación de esta ley no demoremos más la cuestión tenemos todos las ideas claras el gobierno parece que ahora sí cambió de opinión y cree necesaria la elaboración de una ley pues no perdamos más tiempo iniciemos hoy el trámite que estamos convencidos desde nuestra coalición que el resultado será del gusto de todos y sobre todo será útil a nuestra sociedad

hoy nos podríamos poner

hoy si no hubiese regates partidistas y maniobras en corto

si hoy hubiese voluntad podríamos tener una ley de memoria histórica antes de que termine esta legislatura

iniciativa de elkarrekin podemos de noviembre de dos mil diecisiete rechazada

un par de meses después asumimos solicitar un informe sobre políticas públicas de memoria histórica en euskadi entendiendo que se podrían desbloquear las cosas

estructura legislativa integral para unificar y armonizar las políticas de memoria histórica en euskadi ley integral el informe se queda en el cajón

en la comisión de derechos humanos para evaluar las conclusiones del informe cuestionados por nuestra tres grupos nos mostramos favorables a acometer la tarea de dotarnos de una ley el pp ya sabemos niega todo tipo de reconocimiento a estas víctimas

no existen no merecen reconocimiento y reparación y no pasa nada es un escándalo pero nadie le reprochará esta actitud ramírez escudero era el portavoz del pnv en aquella comisión interpretó que y cito es un informe que no resuelve absolutamente nada y de cuya lectura no se puede deducir el hecho de que recomienden que haya una ley que se haga una ley de memoria histórica en euskadi

concluía que nosotros no estamos en contra taxativamente como para decir que no a una nueva ley pero la vemos innecesaria estas eran sus palabras

pp y eaj pnv en contra

asume traernos una propuesta en forma de iniciativa legislativa popular no pueden alegar desconocimiento señores del pnv

en el mundo promueven una iniciativa legislativa sobre la memoria histórica en euskadi el deia la plataforma vasca contra los crímenes del franquismo promoverá una iniciativa legislativa popular para que el parlamento elabore una ley para la memoria vasca gara

promoverá una ilp contra los crímenes del franquismo enfrentar semejante esfuerzo por parte de una iniciativa popular no es un capricho

tiene su parte buena interpreto ya que crea opinión desde la base se hace pedagogía sobre la importancia de la memoria histórica

activa socializa lo que para mí es un valor parece ser que para el pnv ha sido una molestia porque erosiona el monopolio que ustedes creen tener sobre la memoria ante

saltan las alarmas y se reúne el comité de crisis se pone en marcha gogora a la carrera se contrata un experto para elaborar el borrador de un anteproyecto dicen que además con una cláusula de confidencialidad por cierto algo que tengo que solicitar información al respecto

registra la iniciativa el tres de julio en este parlamento es entonces

para anunciar que la ley ya la traen ellos nos aseguran que la traerán rápidamente porque el texto está muy avanzado sin embargo

de gobierno hasta hace veinte días y no se lleva a la dirección de gogora hasta antes de ayer

y efectivamente el señor erkoreka firmaba este dictamen en contra de que se tome en consideración esta propuesta porque decía que la ley tiene inconvenientes y déficits

que aunque no son coincidentes al cien por ciento tienen muchos elementos en común por qué rechazar entonces su tramitación ustedes

desde los dos grupos que sostienen al gobierno las enmiendas que deseen viendo que esto no va con el pp entre el pse y el pnv además tienen una mayoría cómoda si es que están a bloque en este tema para aprobar sus enmiendas para llevar a esta tramitación sus posiciones porque aquí también hay un

la ciudadanía organizada no puede realizar enmiendas los grupos parlamentarios sí

contentar con hacer alegaciones al anteproyecto es decir meras comparsas es este el papel que se le otorga a la

contra los crímenes del franquismo recibió el premio de los derechos humanos

estuve allí y creo que fue un gran día y esto me obliga a hacer un par de reflexiones

a ese premio cuál es la lógica del galardón asegurarse la adhesión a crítica del galardonado tal vez pensaban que mientras operaban

no molestarían todo para las víctimas del franquismo sin las víctimas

si tratan así a una asociación reconocida con el mayor galardón a los derechos humanos en este país no quiero imaginarme cómo lo harán con una organización que no lo tenga esta actitud muestra una desconfianza aún más muestra un desprecio absoluto al asociacionismo en general

de crímenes del franquismo en particular ez da

hau zabaltzen denerako si como parece se rechaza la iniciativa que hoy hemos traído elkarrekin podemos y nosotros

sobre las indemnizaciones que se deben otorgar a las víctimas del franquismo

para el debate legislativo y no se postergue aún más ad calendas a dos mil veintiuno dos mil veintidós para que se pueda dar una indemnización

en el cual cada vez quedarán menos víctimas a las que reconocer a las que reparar y a las que indemnizar

en la exposición de motivos de la que iba a ser su ilp que si esta sociedad desea realmente superar un drama como fue el golpe militar del treinta y seis

sobre las ruinas de la convivencia se hace necesario restablecer la verdad histórica y dar voz a quienes de manera brutal se les privó de la vida

cuando se lanzó a gestionar una iniciativa legislativa que ante la decisión del gobierno de cortocircuitarla elkarrekin podemos

intentamos salvar en este pleno un texto que tal vez no sea el texto de eh bildu o de elkarrekin podemos pero pensábamos que merecía la pena ser debatido que merecía la pena ser tomado en consideración

para una discusión legislativa servía para dotarnos de una ley imperativa

y la reparación a las víctimas del terrorismo franquista sin dilatar más plazos porque el tiempo apremia hoy se votará avanzar o dilatar plazos hoy se votará ponernos en marcha o postergarlo todo acabará habiendo una ley

lehendakari consejero consejera señorías buenos días de nuevo desde luego que hay que construir una memoria cuando el odio se impone en un momento determinado de la historia

para no olvidarnos de lo que generó de lo que provocó de lo que causó ese odio y el odio se impuso en nuestra sociedad

y también se propagó el odio con la presencia de eta y del terrorismo y su proyecto totalitario del que aún siguen sus consecuencias y bien lo vemos como

quieren imponer el odio y lo manifiestan con violencia con ataques al estado de derecho y a la justicia quiero condenar esa violencia

de propagar en aquellas tierras y proclamar nuestra confianza en el estado de derecho en los jueces y en las leyes democráticas y en relación con esta proposición de ley ya manifestamos en algún debate anterior

hemos debatido tres veces sobre lo mismo ya lo manifestamos en las dos iniciativas anteriores de eh bildu y

pero en concreto también esta proposición de ley desde nuestro punto de vista no está bien planteada como memoria histórica una memoria

y no hay más que leer las definiciones del glosario terminológico pero en cualquier caso como este debate

a ese análisis el gobierno vasco nos ha anunciado un proyecto de ley conocemos hemos podido ver el borrador que

trabajaremos hay un criterio del gobierno y entendemos que será mejor trabajar sobre el borrador sobre el proyecto de ley cuando

el gobierno a este parlamento un proyecto de ley se acompaña de informes de legalidad del informe de la cojua de la oficina económica veremos también las alegaciones que tiene ese borrador y ese anteproyecto y lo que sea el proyecto de ley o sea que entendemos que como seguridad jurídica y como seguridad legislativa y parlamentaria

y mucho mejor trabajar sobre ese proyecto y sobre ese documento legislativo nosotros así lo entendemos y trabajaremos es decir también hay criterios de expertos

con los análisis como si hace falta una ley integral si no hace falta si no es necesaria

que mejorar o que rellenar o que ampliar la ley cuatro barra dos mil catorce la ley del instituto de la memoria

hay un elemento de análisis también ese criterio de expertos también ha sido interesante importante ese criterio de expertos hablaba sobre todo sobre fortalecer lo que ya se

caminando el asunto en cualquier caso oyendo algunos discursos es que parece que no se ha hecho nada en relación con las políticas de memoria

es que no se ha hecho nada no han existido normas no han existido leyes

no han existido análisis de lo que ha pasado parece que no se ha hecho nada parece que estamos

algún planteamiento en relación con lo que pasó con la dictadura con la guerra civil y se han hecho muchas cosas y ahí están iniciativas normativas ahí están

importante que todavía está en funcionamiento que es una ley para toda españa parece que queremos compartimentar que sufrimos o que sufrieron

y en conjunto en relación con lo que pudo pasar en muchos momentos y hay una ley de memoria histórica

parecía por algunos discursos alarmistas no se había hecho nada en ese sentido nosotros consideramos que no es necesaria esta proposición no de ley tenemos elementos suficientes para ese análisis y para la respuesta

que cuelga del presupuesto de lehendakaritza que tiene un importante presupuesto y que establece actuaciones concretas en materia de memoria y de análisis de parte de los acontecimientos que sucedieron en la guerra civil o en la dictadura hay los expertos como vuelvo a decir

políticas públicas de memoria apostaban más que por una ley integral por ampliación o por seguir trabajando sobre la ley que creaba el instituto de la memoria y de la convivencia y ahí está esa opinión

desde luego que sería un sarcasmo aprobar

de la mano de los que no consideran una memoria reciente del terror y del odio que causa eta

aprobar una iniciativa de alguien que se acuerda de la memoria histórica
y que no se acuerda de la memoria reciente muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

gracias señora presidenta buenos días lehendakari no está buenos días

representes de las asociaciones y plataformas memorialistas señorías egun on guztioi bien

un voto coherente coherente no solamente con nuestra notoria posición en torno a la memoria histórica si no también coherente con los mandatos de esta propia cámara los aprobados por abrumadora mayoría y hoy más allá del resultado de esta votación es lo que los socialistas queremos volver a destacar efectivamente ya se ha dicho por parte del señor hernández

los dos proponentes y los dos grupos socios de gobierno acordamos encargar un informe a gogora para la identificación de las necesidades

de políticas públicas en favor de la memoria histórica aquellas que podríamos mejorar sobre las ya realizadas y dentro de nuestro ámbito competencial y como recordarán

a partir de ahí y en un posicionamiento plena y constantemente defendido por mi grupo abordamos la redacción de un borrador que tuviera en cuenta tanto el marco normativo estatal iniciado con la ley del gobierno socialista de españa en el año dos mil siete así como las actuaciones para su desarrollo

al objeto obviamente de desplegar un marco legislativo integral este borrador como saben también se ha dicho se encargó a un grupo técnico de reconocida experiencia en el desarrollo normativo en otras comunidades autónomas y en el que hemos estado trabajando intensamente el texto se ha remitido

y por tanto está abierto a cualesquiera mejoras en su tramitación previa incluida aquellas aportaciones aportaciones

todas las asociaciones y plataformas memorialistas a las que desde aquí traslado nuestro reconocimiento expreso y que desde luego no se puede

y que hay que recordar que estas asociaciones memorialistas paralizaron su iniciativa legislativa cuando supieron que el gobierno estaba trabajando en este sentido por tanto

que es lo que los socialistas vascos hemos defendido siempre de manera que el hecho de que hoy los grupos que traen esta iniciativa

esto que los promotores de la ilp habían decidido paralizar no es más que la confirmación también de que las proposiciones que presentaron elkarrekin podemos en

después tampoco eran consideradas ni siquiera por los propios proponentes como las más oportunas en cualquier caso en todos los debates hemos

y esto es que ratificamos nuestro compromiso inexcusable con el reconocimiento y reparación de quienes sufrieron asesinatos persecución

un compromiso el socialista que va avalado como he dicho antes por la elaboración de la ley de memoria histórica del dos mil siete que consiguió encauzar

ramón jáuregui un compromiso que también se constata en su desarrollo en euskadi desde el departamento que dirigía entonces consejera idoia mendia en el gobierno socialista del lehendakari

un compromiso que también está en el impulso que dimos al proyecto de gogora y un compromiso que

incluidos los debates de política general porque para nosotros este asunto es

siempre hemos dicho que es necesario culminar todo lo que suponga reconocimiento y reparación de estas víctimas y efectivamente ya lo han dicho antes y es mucho más

reto democrático y estamos viendo su dimensión en toda su plenitud durante años vimos que el gobierno del pp entre dos mil doce y dos mil dieciocho

la ley de memoria histórica pero ahora el desafío es incluso mayor no solamente se trata de un desprecio absoluto a las víctimas con expresiones que da vergüenza repetir

los principios de la dignidad y la memoria y nosotros aquí en esta cámara no podemos permitir que eso suceda así

perseguidos y esclavizados durante el franquismo efectivamente este señor hernández lo ha dicho pero lo que sí que hay que ratificar aquí es que

grupo de esta cámara y somos conscientes de que las víctimas siempre sienten

pero tendríamos que mirarnos todos hacia dentro ahora el mensaje importante para las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista

la determinación de al menos una amplísima mayoría de esta cámara esperamos que sea unanimidad ojalá para culminar una ley vasca que complemente la estatal

para que recuperen la dignidad de la que les pretendieron despojar y si trabajamos en ello

hay tiempo hay tiempo señor arzuaga

año y en este parlamento existen sobradas experiencias de voluntades compartidas que se fraguan en leyes en muy poco tiempo así que desde nuestro grupo

demagogia y frente a la demagogia reconocimiento

trabajo discreto y máximo consenso sin alardes ni protagonismos así hemos actuado hasta ahora porque este país sí ha actuado

pionero con la ley de víctimas de violaciones de derechos humanos conocida como abusos policiales pionero en una forma de proceder que busca el máximo consenso en torno a una materia sensible como es la memoria histórica y esta proposición de ley ha entrado como elefante en cacharrería mucho ruido pero

es más lo ha evitado consciente y voluntariamente hasta el punto de que nosotros por lo menos no otros hemos tenido acceso a todos los textos a través de la prensa

y además en periodo electoral ruido no solo eso el elefante pretende hacer creer que hasta la fecha no se ha hecho nada en euskadi en esta materia

ignora el compromiso de años en las asociaciones e instituciones ignora las leyes aprobadas en este parlamento ignora las indemnizaciones abonadas a quienes sufrieron prisión

y mil novecientos setenta y ocho ignora incluso la ley de creación del instituto gogora aprobada en esta cámara ignora toda su actividad durante casi cinco años

siempre desde el respeto a quienes actuaron con anterioridad desde la discreción y desde el máximo consenso esta es la actitud que merece una memoria histórica auténtica y una reflexión más al hilo de lo que venimos escuchando estos últimos días y semanas

con quienes la manipulan hasta el extremo de equiparar a los gudaris y milicianos con los terroristas de eta es muy difícil compartir acuerdos

que defendieron la libertad la democracia y nuestros derechos frente a los golpistas son los mismos que quienes quisieron imponer sus ideas asesinando con tiros en la nuca o bombas lapa mantener esta actitud

una moción para debatir sobre las infraestructuras de logística en este país presentamos esta moción porque el gobierno no tiene una estrategia en esta materia

y sin embargo está financiando inversiones con dinero público sin medir su necesidad

que si bien son legítimos no tienen por qué coincidir con el interés público y por lo tanto no nos gustaría que el debate hoy

o no sino si necesitamos si tenemos que poner dinero público por qué tenemos que poner dinero público para qué tenemos que poner dinero público y con qué beneficio esperado tanto económico como social gure taldeak ez du ukatuko logistikaren garrantzia gaurko

handiak que necesitemos infraestructuras logísticas está fuera de duda a día de hoy la cuestión es cuántas dónde

planificación se necesita una previsión y se necesita una estrategia que este país no tiene no tenemos una estrategia porque en dos mil catorce la

fue una estrategia de papel una estrategia presentada en una página web que no pasó por el consejo de gobierno y que nunca se ha evaluado su cumplimiento cinco años después

y no tenemos la estrategia y tampoco tenemos esa marca

fue registrada por una empresa privada en el año dos mil quince a nombre de una sociedad de gestión patrimonial con sede en el polígono salcedillo

si nuestro gobierno no tiene una estrategia logística y se ha dejado quitar la marca entonces lo que nos tenemos que preguntar por qué estamos invirtiendo dinero público sin tener claro en qué lo gastamos cómo lo gastamos para qué lo gastamos y dónde lo gastamos eta estrategiarik ez dugunez

ez da estrategia bat sartzen que no tengamos una estrategia logística tiene varias consecuencias y las voy a poner de manifiesto con tres ejemplos prácticos las tres plataformas logísticas la de jundiz la de arasur y la de pasaia irun

cuya primera fase consistente en la ampliación de la

se ha puesto en marcha recientemente por el ministerio de fomento

intermodal el gobierno vasco ha corrido y yo diría que ha corrido para nada para recalificar cuarenta y cinco hectáreas de usos agroganaderos para

lo que no se ha dicho y no se ha caído en cuenta o no sea querido caer en cuenta es que esa terminal intermodal no puede nunca funcionar si no se termina la y vasca o

con el ancho europeo cosa que tampoco está planteada por no mencionar que se necesitan adaptaciones en la red francesa para que la famosa autopista ferroviaria de jundiz a francia sea una realidad es decir planteamos una infraestructura y corremos para ponerla en marcha sin que luego podamos saber cuándo podrá funcionar

segundo ejemplo la plataforma arasur aquí también se plantea

a pesar de que hay una tercera plataforma ferroviaria en pancorbo que es el puerto seco del puerto de bilbao a esto lo calificaría como dar dinero para nada

es propiedad en un ochenta y ocho por ciento de una sociedad araba logística que a su vez la mitad del capital está en manos de una socimi que paga un cero por ciento de impuesto sobre sociedades

a sabiendas de que ahora está desarrollando otra en jundiz y otra en pancorbo

lo único que estamos haciendo es dar dinero a una sociedad que no es rentable que no lo ha sido y que no lo será sin tratar de evaluar cuál va a ser el rendimiento que consigamos

de esa inversión la plataforma arasur perdió tres millónes en dos mil trece dos coma tres millónes en dos mil catorce uno coma cinco millónes en dos mil quince uno coma cinco millónes en dos mil dieciséis y en dos mil diecisiete

millónes de euros y todavía no sabemos para qué va a servir

un tercer ejemplo el de la plataforma lezo gaintxurizketa al lado del puerto de pasaia

hace veinte años pensando en los tráficos de mercancías de aquella época se diseñó pensando en dar servicio al puerto exterior de pasaia que es una infraestructura que ya ha quedado

y lo que más importa y a esto definiría que es destruir para nada ciento ochenta hectáreas de suelo rural con veintidós caseríos para poner otra terminal ferroviaria más esta vez con doce vías

la pregunta es a qué dará servicios si el puerto de pasaia cada vez tiene menos tráfico si es un puerto en declive por lo tanto

si necesitamos infraestructuras logísticas o no sino cómo hacemos para que esas infraestructuras se planifiquen con una racionalidad suficiente y con la suficiente transparencia

que nuestra moción que hemos transaccionado con el grupo popular vaya en el sentido de que haya una estrategia clara y nítida de lo que necesitamos de lo que no necesitamos

y a qué no le damos dinero porque en los tiempos que están en los tiempos que corren no está

dinero para tirar dinero en infraestructuras que luego no vayan a servir para el cometido para el que se diseñaron eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna

gracias señora presidenta señorías al hilo de la iniciativa que presentaba el grupo podemos

de una manera muy voluntariosa decía que se actualice la estrategia pero es que realmente hay que reconocer señor becerra que no hay estrategia

hizo a esa moción dice que efectivamente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a elaborar la estrategia

y a presentarla en esta cámara para que la conozcamos también décimos que lo que debe ser y siempre ha sido

con estudios previos que marque objetivos planificación medidas a ejecutar y medidas para su posterior revisión y evaluación con plazos y con presupuestos pero es que esta estrategia marca

no sabemos muy bien qué es no tiene texto no tiene página web está vacía prácticamente pero sí presupuesto

damos dinero a aquel que nos aparece en cada momento creo que el presidente del puerto de bilbao tendrá que explicar por qué

todos los años en base a este logo y tantas y tantas cosas

se ha puesto una caja con dinero se ha hecho un logo y ahí décimos que tenemos una estrategia

como lo vendemos la realidad y yo estoy de acuerdo con todo lo que ha expuesto aquí el señor becerra que tenemos una ubicación geográfica nos sitúa en una posición de referencia en la planificación logística de enlace

de estructuras logísticas lo ha dicho usted tenemos polígonos logísticos

y luego tenemos las estructuras los puertos de bilbao y de pasajes los aeropuertos la nueva red ferroviaria la nueva red ferroviaria

llevamos veinte años esperando la nueva red ferroviaria claro

si tenemos paralizada la red ferroviaria verdad porque la ha elegido el gobierno

nacionalistas vascos y por eso han vuelto a paralizar la red ferroviaria con lo cual

en el aire y tenemos en el aire todo ese movimiento logístico porque efectivamente el ferrocarril tiene que formar una parte importante de esta estrategia

modos y maneras de transportar las mercancías especialmente y todo esto como usted decía señor becerra requiere una coordinación y una coordinación además con el ministerio el ministerio sí hizo en el dos mil trece una estrategia logística

la logística y la estrategia y creó el foro de las comunidades autónomas y creó el foro de los entes logísticos y de los actores en logística del sector y qué dice esa estrategia en esa estrategia están trabajando

desarrollo de normativa específica de la logística hay muchos déficit el sector pide

modificaciones en esta normativa nos tenemos que equiparar al resto de europa

la elaboración del código de buenas prácticas la creación de una ventanilla única para la tramitación

cómo armonizar la documentación requerida en las cadenas de transporte la nacional y la internacional analizar las capacidades de carga

de autopistas ferroviarias claro la optimización de los modelos de gestión en terminales intermodales acuerdos con los sectores logísticos el industrial para potenciar

para ser más sostenibles para ser más eficientes incremento de la competitividad de los puertos

hace veinte años que fuimos a ver ya en otras ciudades cómo se transportaban los camiones con la mercancía con la carga había un interés parecía por aquella iniciativa aquí y hacerlo posible pero es que no que estamos parados que no avanzamos

y seguimos después de veinte años hablando de lo mismo gastamos dinero pero no es de manera eficaz además de no ser transparente no es eficaz por lo tanto lo estamos haciendo bastante mal es mejorable la actuación que estamos haciendo

la página del basque country logistics es espectacular no sé si la han visto valores

para competir así de escueto colaborar para competir no sé si hablan del país vasco si hablan de cataluña si hablan de alemania misión

optimizar la prestación de los servicios logísticos y del transporte en euskadi a través del desarrollo y potenciación tanto de infraestructuras como de plataformas logísticas

punto visión vamos a desarrollar y potenciar y poner en valor la red logística integrada al país vasco punto no existe más esto es el corredor

atraviesa euskadi y está incluido como prioritario en la red de transporte desde dos mil once nada más

volvemos a colaborar para compartir es que así acaba el hub logístico

y nada más esto es lo que hay no hay más y luego nos dice

la enmienda que hacen los grupos verdad nos dicen no no es que

ustedes no se enteran porque es que la estrategia logística está dentro del plan director de transporte sostenible de euskadi dos mil treinta hacemos primero

hacen luego presupuesto gastan luego hacen el plan y luego incluyen la estrategia dicen dentro del plan esto a mí

una cierta decencia y de una manera transparente esa es la enmienda que hemos firmado entre el grupo podemos y el grupo popular creo que es una enmienda de lógica

y que podamos valorarla evaluarla pero por favor

más o menos estrictamente a lo que decía la enmienda

y termina escuchando cosas que poco o nada tienen que ver decía en fin yo creo que si ustedes quieren más concreciones a lo que les invitaría es a ejercer su labor de oposición a solicitar las comparecencias y a que la consejera el viceconsejero o quien ustedes estimen oportuno venga a este parlamento a darles las explicaciones que deban o a transmitirles esa información por escrito

como gobierno pero parece que en los últimos tiempos se está poniendo de moda venir aquí al parlamento

presentando una cosa viniendo a hablar de otra que puede tener algo que ver pero que no se ciñe estrictamente con lo que dice esa proposición no de ley sin ton

socavar a este gobierno pues bueno pues ustedes verán pero yo creo que la consejera fue perfectamente clara

interpelación que le realizó el señor becerra y fue perfectamente clara en la respuesta a la única pregunta que se le ha realizado al respecto en definitiva

una estrategia y que esa estrategia está incorporada dentro de un plan y qué hay de malo en eso acaso una estrategia no puede incorporarse dentro de un plan

y se establecen unas medidas para lograr esos objetivos acaso eso no es de por sí una estrategia la consecución de unos objetivos

o menos les puede parecer más acertado menos acertado

menos eficiente más sostenible menos sostenible pero no nieguen algo que es evidente y que la consejera ya ha puesto en su conocimiento en definitiva

que esto resulta una oportunidad por supuesto que es una oportunidad yo creo que ni a este gobierno ni a nadie se le escapa que euskadi está situada

clave que tiene un enclave estratégico y que es la puerta la conexión de la península

y que eso supone una oportunidad y que esa oportunidad hay que aprovecharla y que creo que este gobierno no solo este gobierno los gobiernos anteriores también han intentado poner en valor

alguna de ellas a las nuevas oportunidades que surgían a las nuevas circunstancias que surgían y con el paso del tiempo seguirá siendo así

a los objetivos que se planteaban pero sobre todo a los retos estratégicos que tenía este país en esta materia al igual que lo ha hecho en otras en fin yo creo que la actividad

a esta cuestión ha sido permanente por parte como digo no solo de este gobierno sino también de los gobiernos anteriores y todos los objetivos que se planteaba

y que también están reflejados en la transacción que ha firmado con la señora lópez de ocariz ya se están cumpliendo es que ustedes no han descubierto la pólvora eso es algo que ya se está todos esos objetivos y también los medios para obtener esos objetivos están en ese plan y este gobierno ha sido transparente este gobierno tiene ese plan publicado está perfectamente accesible para todos ustedes como decía les puede gustar más o menos pero eso está

la transacción que ustedes han firmado están también perfectamente recogidos el fomento del desarrollo económico sostenible responsable inteligente la accesibilidad universal un nuevo equilibrio en los medios de transporte la potenciación

estratégica de euskadi en la unión europea el fomento y el uso de un

eficiente sostenible un transporte público integrado también si es que va mucho más allá de lo que ustedes traían aquí no sé

incorporada en ese plan que tenga ese plan ya actuaciones

como al transporte privado que se mencione y se desarrolle una colaboración interinstitucional como también ha venido siendo

no solo entre el gobierno vasco y las tres diputaciones forales sino entre el gobierno vasco las tres diputaciones forales y el gobierno de españa incluso también

en fin no sé las plataformas logísticas están perfectamente planificadas de acuerdo a la estrategia que tenemos como país y también de acuerdo a las estrategias

europea no sé yo creo que es algo que está claro meridianamente claro y que además incorpora

no solo las planifica pensando única y exclusivamente en dar un servicio al transporte extranjero

va más allá y supone una oportunidad para desarrollar nueva tecnología que se hace en euskadi que es un valor añadido que también tenemos no solo nuestra posición estratégica geográfica sino nuestra posición estratégica

con ese valor añadido que tenemos en euskadi qué hay de malo en eso

el hecho de que estemos colaborando entre instituciones que exista también una colaboración público privada para desarrollar estas infraestructuras es algo que forma parte

es mirárselo un poquito entre ustedes porque hoy han firmado una transacción que como decía no dice nada nuevo sobre lo que ya

resulta más extraño es que dos visiones tan opuestas sobre el futuro de las infraestructuras y sobre el futuro de ciertas cuestiones a la infraestructura y al transporte en euskadi haya encontrado un punto de acuerdo en la nada

andrea legebiltzarkideok egun on guztioi señor becerra no me lo tome a mal pero yo estaba convencido de que esta moción no iba a llegar a este pleno

la interpelación de origen allá por mayo en segundo lugar porque la consejera a mi humilde entender dio cumplida respuesta a las dudas que usted tenía aunque parece que las sigue teniendo fundamentó usted su interpelación y hoy esta moción en la inexistencia de una estrategia logística y solicita que se elabore una nueva

no les gustan nuestras enmiendas cuando instamos al gobierno a seguir haciendo a seguir trabajando a seguir mejorando y además lo entiendo

un punto de encuentro pero en este caso han ido ustedes más allá

y que lo hagan a mi gusto sin oposición sin elección como no me gusta no existe y hagan otro nuevo por favor y esto señor becerra no es así no es así

insisto yo creo que usted y yo podríamos encontrarnos en el matiz en lo que se puede mejorar

en cómo hay que adaptar las infraestructuras en el tiempo en el espacio en el momento pero claro cuando usted parte de una realidad inexistente

se achica al mínimo el problema es que creo que me temo

lo sabe es consciente y con ese discurso

por cierto han llegado ustedes hoy al culmen de la transacción

no sé si me tengo que quedar con la actualización del señor becerra o con la elaboración de la señora lópez de ocariz espero que nos lo expliquen en el segundo en cualquier caso

no les voy a sorprender vamos a votar no en cualquier caso vamos a votar que no

a quien solicita que se elabore una nueva

y al que solicita que se actualice le vamos a votar que no porque nos parece que es muy complicado actualizar la actualidad

existe una estrategia en materia logística se lo explicó la consejera con pelos y señales allá por mayo una estrategia que tiene su origen y su punto de partida en esa marca basque country logistic de la que ustedes hablan presentada en dos mil catorce y que define los principios fundamentales de la acción del gobierno a saber transporte mixto competitividad de nuestra infraestructuras y la intermodalidad

ni este gobierno ni el anterior estos principios se han definido en planes concretos

más rico más amplio en el que también se incluye el transporte de pasajeros y que se ha venido en denominar

actuaciones criterios plazo y evaluación en el plan director de transporte sostenible dos mil treinta aprobado en dos mil diecisiete de dos mil diecisiete a aquí ha llegado

algo este plan se lo explicó la consejera yo no voy a entrar en detalles pero incluye

todo en el cuarto punto y también hemos avanzado y usted lo sabe bien

incluyendo todo el área de transporte en la ley de sostenibilidad energética del país vasco por ejemplo

ustedes esa estrategia que dicen que no existe con objetivos

variante sur ferroviaria arasur por cierto ha puesto usted un ejemplo para qué vamos a invertir en arasur teniendo pancorbo cuando el puerto de bilbao tiene pancorbo para qué se va invertir para que va a invertir el gobierno

el gobierno vasco la diputación foral de álava y casualmente sabe quién el puerto de bilbao ahora que si usted prefiere que

está en su derecho la autopista ferroviaria júndiz plataformas multimodales

digitalización y sostenibilidad ahí tiene los objetivos y tiene las acciones como les digo se ha ampliado el horizonte de actuación de dos mil catorce para dejar de hablar de basque country logistic y comenzar a hablar

mobility y esta política no la puede llevar a cabo única y exclusivamente el gobierno

junto al clúster que en dos mil dieciocho presentó su primer plan estratégico ahí tiene usted más estrategia y más planificación y reciente

así que quizás todavía sea me parece a mí un poco pronto para actualizar la actualidad como le digo por eso les digo que llegan ustedes tarde les puede gustar más o menos lo que está haciendo les puede gustar todo o les puede gustar

estamos en el momento del desarrollo de las medidas que le he enumerado medidas estudiadas analizadas y con criterio adaptadas a las necesidades de este país y de su futuro euskadi debe ser un logístico estratégico en el eje atlántico para el comercio internacional

estamos potenciando un conjunto de infraestructuras que son la clave de un desarrollo económico sostenible que garantiza la conectividad y mejora de la competitividad de nuestro territorio y su tejido económico siempre en coordinación con los agentes implicados

a asumir una posición prioritaria en todo el eje atlántico por donde a futuro circulará un volumen de mercancías que abre oportunidades para el conjunto de la economía vasca tenemos que estar preparados y posicionarnos como un corredor competitivo

a través de conexiones intermodales por eso como ya les he anunciado votaremos en contra de su enmienda transaccional

para que esto se haga a demanda a demanda de las grandes constructoras que son las que demandan más obra pública

números macroeconómicos en eso coincido plenamente con usted nos encontramos ante una no estrategia que es la estrategia más eficaz para hacer lo que se nos demanda por parte de las constructoras

y qué decir en conjunto esa es la situación que tenemos de toda la vida y va a seguir siendo así no me gusta la propuesta porque

plantea que hay que coordinarse con el gobierno de españa y en el país que yo imagino el país que yo siento habría que coordinarse con la mancomunidad

si estamos hablando de una movilidad transeuropea etcétera etcétera creo yo que habría que hacer un diseño de país y un diseño de país implica a nafarroa e implica a ipar euskal herria e implica a los tres territorios históricos

esa sería la planificación la gestión y la estrategia que habría que hacer no soy muy amiga de hacer documentos sobre estrategias la verdad que coincido con la señora ocariz la página web sobre la estrategia

esta de basque logistics no sé qué porque le ponemos nombres en inglés para que parezca que tienen

que entras en la página web y es lamentable porque no tiene contenido más allá del titular en inglés no tiene ningún contenido y

y ganar tiempo entonces no entiendo muy bien por qué desde elkarrekin podemos se plantea al gobierno una alfombra roja para que gane tiempo para hacer nadie sabe muy bien qué e invertir dinero público

muy útil tampoco entiendo muy bien cómo se alía elkarrekin podemos en este tema con el partido popular porque es conocida la posición del partido popular

no entiendo muy bien el partido popular qué hace planteando una estrategia planificada en función de números macroeconómicos cuando realmente en los sitios donde ha estado gestionando no ha habido ni planificación ni nada o sea la sistemática ha sido exactamente la misma

grandes constructoras y política e inversión pública

muy poderosos y a veces resulta difícil y complicado decirles que no pero se puede decir perfectamente que no de la iniciativa

no traduzco una no construcción un repensamiento

a mí me hubiera gustado que elkarrekin podemos hubiera planteado una moratoria en todas las infraestructuras que ya están planificadas porque creo que es el momento de parar

creo que es el momento de repensar qué infraestructuras necesitamos es el momento de actualizar los números macroeconómicos y las previsiones que a día de hoy sabemos que están

y creo que sería mucho más osado y mucho más coherente por parte de elkarrekin podemos que planteara una moratoria y no tanto esta iniciativa que al final a lo que lleva es también

de un montón de infraestructuras que ya están previstas en diferentes fases pero que ya están previstas y no un cuestionamiento de las mismas si bien entiendo que la intención es esa pero el modo de formularlo y el modo de plantearlo creo que no ha sido el más correcto

no me parece que sea inteligente plantear tácticamente al gobierno que tenga seis meses para legitimar todo lo que quiere hacer y plasmarlo en un documento

con plazos luego acaban no haciéndose acaba el parlamento regañándoles pero el gobierno sigue haciendo

porque tiene la legitimidad para ello y tiene la vinculación con respecto a las decisiones del parlamento como la que tiene

con esta iniciativa si se aprobara esta iniciativa lo que haríamos sería legitimar al gobierno

porque va a plasmar en un documento todas las infraestructuras que ya tiene previstas hacer algunas ya en fase de licitación otras en fase de construcción

que es el antidocumento que yo políticamente defiendo por tanto no entiendo por parte de elkarrekin podemos en política de infraestructuras no entiendo la posición

que sigue ofertando una alfombra roja al gobierno para que este gobierno siga haciendo y deshaciendo lo que quiere en un país donde no cabe ya un metro cuadrado más de cemento

vaya por descontado que no vamos a votar a favor de la enmienda a la totalidad planteada por los grupos que apoyan al gobierno pero por eso entiendo que

esta propuesta transaccional del partido popular y elkarrekin podemos besterik ez eskerrik asko

yo entiendo que en este parlamento las alianzas las hacemos sobre textos escritos también sobre cuestiones ideológicas no cabe duda pero generalmente sobre textos escritos la postura de elkarrekin podemos es tan crítica con estas infraestructuras como la de eh bildu

no hablaré solo de la plataforma lezo gaintxurizketa sino arasur pancorbo todas las que queramos ver

hubiera puesto por escrito y hubiéramos llegado a un acuerdo ustedes y nosotros y a lo mejor no hubieran entrado otros grupos es fácil

se plantea una alternativa la cuestión aquí no es solamente si somos críticos o críticas con las infraestructuras que nuestro grupo lo es sino qué hacemos con el dinero público que invertimos en estas infraestructuras

a mí la verdad es que no me parece mal que el grupo popular en este caso comparta un análisis crítico sobre qué estamos haciendo con este dinero porque cuando el gobierno habla de colaboración público privada y ustedes del grupo popular se lo compran

no tener estrategia o tener una estrategia solamente en una página web para poder dar dinero público

por el país sean necesarias no sean necesarias sirvan para algo o no sirvan para algo

preguntarle a la consejera exclusivamente por qué

solo un año después esa marca es registrada por una empresa privada

a su nombre por una sociedad patrimonial domiciliada en el polígono trapagaran polígono salcedillo de trapagaran eso hubiera sido desgastar al gobierno

pero evidentemente no estamos solo para eso no estamos solo para eso que también a veces cuando no queda más remedio estamos para plantear soluciones y alternativas

leyó el famoso plan director de transporte sostenible dos mil treinta señor grajales claro que lo leímos y en ese plan no hay ni un solo

del país del país lo que se ha hecho en ese plan es recoger la estrategia del sector privado logístico

la estrategia del sector privado y automáticamente darle dinero para que haga lo que quiera

fíjese porque no hay demanda suficiente para todas las plataformas logísticas que se están poniendo no hay demanda suficiente estamos creando plataformas para que compitan unas con las otras todas ellas financiadas con los mismos fondos públicos y le voy a poner un ejemplo en jundiz nuestro grupo sí es favorable a una autopista ferroviaria una autopista ferroviaria que saque los camiones y los lleve al ferrocarril pero resulta que en jundiz se plantea sacar ciento treinta mil camiones al año

y en arasur se plantea quitar cuatrocientos veinte mil toneladas son las mismas toneladas

las mismas toneladas estamos duplicando infraestructuras entonces tenemos un plan director de transporte que no es coherente y además tenemos

las mismas cantidades de mercancías

que transportaba e los años sesenta y ahora no transportamos esas cantidades se plantean

de toneladas en el puerto de pasajes dentro de siete años cuando ahora mismo está en menos de tres está en menos de la mitad están ustedes destruyendo suelo por destruirlo

todos los años se está enterrando dinero público dinero público dándoselo a una sociedad que no paga impuestos que no paga impuestos

arasur tiene que competir con pancorbo no mire a elkarrekin podemos mire a los socialistas

y dígale usted a los socialistas por qué invirtieron en pancorbo y no diez kilómetros más aquí en arasur pero ahora el resultado es que tenemos tres plataformas

otra en arasur y otra en jundiz qué hacemos cargamos las mercancías en pancorbo

para que todas tengan actividad esto es un despropósito esto es un despropósito de dinero público y en eso deberían centrarse y no en decir

es sorprendente escucharle me dice que vaya a preguntar que pida comparecencias usted preside una comisión

ocho meses diez meses estamos viendo ahora comparecencias de febrero de marzo

creo que por favor mire lo que estamos y hemos venido a decir aquí no es si esta infraestructura sí esta no

logos y una cosa que llaman estrategia que no existe

ahí estamos que las estructuras que tiene el gobierno para hacer política esta es una mentira

a fin y utilizan estas herramientas para hacer otras cosas que nada tiene que ver con la logística

para bueno desarrollar otras actividades

señor grajales a no sé qué año le voy hablar de septiembre de dos mil diecinueve

lo siguen utilizando como tal boletín oficial del país vasco

en la que dice que en este sentido el departamento de desarrollo económico e infraestructuras del gobierno vasco en el desarrollo de las acciones de promoción

dice no ya no operamos así ahora es otra cosa no no ahí está y lo siguen utilizando y para qué utilizan eso para hacer un convenio

estamos en los eventos esta es la plataforma que utilizan para los eventos claro

al presidente del puerto de bilbao que es el que nos va a buscar ferias y eventos donde ir esto tiene otro nombre

otras cosas por lo tanto

es interesante para el gobierno vasco estar en un punto y utilizan esto no es para una promoción

ni para una organización ni para una planificación de actuaciones no es una tapadera lo ha entendido pues eso es

eskerrik asko mahaiburu anderea ha vuelto a quedar claro

en la réplica absolutamente nada nuevo yo les he hecho una serie de preguntas les he dicho a ver

dentro de ese plan en fin ustedes a lo suyo unos

lo más importante de todo esto el registro de la marca qué se ha hecho con esa marca todo basan ustedes todo en eso se lo ha dicho el señor grajales aquí tuvieron a la señora consejera

se lo dejó bastante claro el que lo haya querido entender bien el que no lo haya querido entender es su problema pero ahí está todo no vengan ahora a justificar a través de esta

y yo se lo repito y se lo reitero que si quieren aclaraciones sobre infraestructuras concretas y no creo que la señora consejera tenga ningún problema en venir a hablarles del tren de alta velocidad

o de las plataformas logísticas o de la situación y el funcionamiento de los puertos que hay en euskadi o incluso de la ley de movilidad sostenible que ni tan siquiera se han preocupado en mencionarla y es otra cuestión que me parece que es de indudable relevancia fíjense ustedes la marca y qué hace este gobierno con el dinero

que le deben de preguntar a la consejera y a raíz de eso podrán opinar con conocimiento de causa

y llegando a acuerdos absolutamente antinaturales en una cuestión en la que tienen visiones absolutamente

empezando por todas las cuestiones que les he puesto aquí encima de la mesa empezando por eso porque no iban a estar ustedes de acuerdo en ninguna de las cuestiones en ninguna de las cuestiones

la página web está vacía y en qué invierte el dinero este gobierno pregúnteselo pero hombre señora lópez de ocariz que venga usted aquí

en qué malgasta el dinero este gobierno qué uso hace del dinero público este gobierno cuando es usted representante del partido popular me parece cuanto menos bastante cínico y bastante hipócrita con todos mis respetos después

el gobierno del partido popular con el dinero público de todos los españoles con el dinero que ha utilizado el partido popular desde el gobierno para poner en marcha infraestructuras

absolutamente para nada con el despilfarro de dinero público que ha invertido en sociedades públicas el partido popular isiltasuna que no sirven

desde el minuto uno para llenar la caja b de su partido que vengan ustedes a decirnos a nosotros qué uso hace este gobierno del dinero público me parece
cuanto menos un despropósito isiltasuna isiltasuna disculpen pero

el mismo respeto entiendo que no les guste entiendo que no les guste

con una deficiente gestión de un partido que está corrupto de arriba abajo entiendo que no les guste pero es su realidad mírense al espejo

que bastante tienen ustedes con lo suyo en cualquier caso

lo que tampoco le voy a consentir señora lópez de ocariz es que utilice usted este punto

entre otras cosas porque ustedes están trayendo a este pleno iniciativas que llevan más de año y medio registradas y cuando usted sabe de sobra que cualquier comparecencia que afecta al gobierno en lo que respecta a la comisión que yo presido

y que si existe algún problema en la mayoría de los casos me pongo en contacto con ustedes para darles las explicaciones oportunas que en la mayoría de los casos

en lo que respecta al cien por ciento de las comparecencias que ustedes solicitan sobre otro tipo de entidades asociaciones o personas físicas la mayoría

sino por la imposibilidad o el nulo interés que tienen esas personas por venir a comparecer así que no ponga por favor en tela de juicio mi labor como presidente porque no se lo consiento

no tiene ningún tipo de argumento serio para ponerlo encima de la mesa y le digo aquí estamos tratando iniciativas que ustedes hace más de año y medio

tendrán esas iniciativas cuando vienen aquí casi dos años después a traerlas tiene problemas de audición señor sémper pues mire póngase un sonotone y si no le interesa lo que estoy diciendo
se puede marchar isiltasuna isiltasuna en cualquier caso me parece bastante poco respetuosa ruiz de arbulo sémper jauna isiltasuna yo entiendo que les duelan las cuestiones

pero son cuestiones que muchas veces vienen derivadas de su irresponsabilidad de su falta de criterio y su falta de seriedad a la hora de proponer las cosas muchas gracias eskerrik asko andueza jauna

en fin a mí me gustaría sosegar un poquito el debate y volver a tema aunque he de confesarles que ya no sé muy bien cuál es el tema

las infraestructuras logísticas porque si empezamos a hablar de ese tema probablemente los dos grupos que han firmado una transacción empiecen a pegarse entre ellos también y ya es lo que nos falta esta mañana porque obviamente no coinciden absolutamente en nada

no sé si hablar de branding del valor de la marca de las páginas de internet

no sé si hablar de corrupción y no sé si hasta tenemos que hablar de geografía

porque en cualquier caso yo no le he mirado a usted señor becerra

en que contamos con pancorbo dentro de nuestro ámbito de actuación yo hasta la fecha no y le diré que

es en arasur en arasur que por cierto en este verano ha llegado al cien por ciento de ocupación

en colaboración con el resto de instituciones públicas sin nombrarlas porque debemos trabajar con aquellas que nos son más cercanas y con las que no porque

su gobierno allá por el dos mil trece cuando sacó el plan de logística de españa se le han olvidado dos cositas los compromisos concretos respecto a júndiz

dos mil trece entre dos mil trece y dos mil diecisiete por eso se le habrán olvidado porque qué hicieron nada nada cero compromisos adquiridos cero tuvo que venir

para incluir que aquello que ya estaba firmado se incluyese en los presupuestos generales del estado y así poder llevarlo a cabo de una vez ya ve señor becerra con quién firma usted las cosas por eso no entraba en los detalles claro

a mediados de dos mil dieciocho que se produce la moción de censura al señor rajoy hay año y medio para cumplir con compromisos también

así que nos ha tenido que leer todo lo que dice el plan de logística menos lo que tiene que ver con los compromisos concretos que ustedes adoptaron con este país y que incumplieron

que este gobierno en seis meses con unas elecciones generales de por medio

en seis meses en fin así tendrá que ser en cualquier caso como les digo vamos a sosegarnos

nosotros gobierno seguirá gobernando como mejor sepa y no tenga ninguna duda que este país a pesar de ustedes
está en buenas manos muchas gracias señora presidenta eskerrik asko grajales jauna

y de su fundamental contribución al desarrollo sostenible a la seguridad alimentaria al mantenimiento y su actualización

contar con las mujeres para garantizar el futuro rural resulta imprescindible lo mismo que resulta imprescindible seguir alzando la voz para continuar denunciando las desigualdades y la falta de oportunidades que sufren las mujeres rurales

alto y claro que la igualdad real de oportunidades no será posible hasta que asumamos de manera efectiva el valor y el papel fundamental que juegan en el progreso económico y cultural de nuestros pueblos por eso resulta imprescindible que sigamos apostando con decisiones por fomentar y desarrollar

en los ámbitos social cultural económico y político con el objetivo de que posean un mayor poder de decisión en los hogares en las empresas en la sociedad y en la política